por la consejera de desarrollo económico e infraestructuras relativo al acuerdo entre el grupo catalán tgt y el ayuntamiento de karrantza para reabrir una antigua planta de transformación de productos lácteos y retomar su actividad y más si cabe

y con dificultades para generar su propio crecimiento endógeno resultando en muchos casos necesario buscar trabajo fuera de la comarca

en cualquier caso y con el propósito de avanzar más allá del anuncio realizado

hartzen baldin badegu eta bere ekoizpena es además un valle en el que

muy rural el índice de ruralidad es el más alto y

esango genuke queremos avanzar en la modernización y mejora de la calidad de vida del medio rural evidentemente asimilándola a la que tenemos en núcleos muy poblados desde ese punto de vista este proyecto pretende dos cosas por una parte la reapertura y la puesta en marcha

cerrada y fuera de uso desde hace varios años evitando así además el abandono de unas infraestructuras interesantes eta beste alde batetik karrantzako haranaren

de empleo y para el desarrollo de zonas rurales como comentaba en este sentido decir que los esfuerzos que hemos estado realizando desde el programa de desarrollo rural

de karrantza este proyecto refuerza la apuesta por mantener y desarrollar

y además va a general alrededor de cincuenta empleos beraz

kontuan izanik haietako askok ez dutela oraindik jaso merezi duten aitorpena el gobierno vasco está comprometido con la memoria histórica y considera

celebrado en un contexto de homenaje al general golpista sanjurjo es una demostración de falta de sensibilidad hacia las víctimas del franquismo

este acto contraviene además el espíritu de la ley de memoria histórica las víctimas del franquismo deben saber y saben que las instituciones vascas están a su lado

ez zait txikia iruditzen no me parece una cuestión menor porque

en una de las guerras más cruentas en europa que dejó miles

se encuentran enterrados en cunetas sin haberlos sacado de allá en pocas horas tiene usted la oportunidad de encontrarse

supremo de las fuerzas armadas españolas general de los ejércitos me parece que es el rey de españa me gustaría que le preguntara al respecto qué es lo que piensa el rey de españa de que sus

participen en encuentros como este me parecería interesante pregúnteselo en castellano no en euskera con acento catalán por si acaso

este parlamento instó al gobierno vasco a reforzar la unidad de medio ambiente el grupo de agentes que

en dos sentidos por un lado en incrementar los medios humanos materiales y técnicos de los que disponían y por otra parte en

como con las administraciones locales y forales me gustaría saber qué actuaciones se han desarrollado en el departamento durante estos dos años para dar cumplimiento a este requerimiento del parlamento

urbanismo y medio ambiente dentro de la división de investigación

la persecución como decía usted y la denuncia de los ilícitos penales relacionados con el medio ambiente

resto de las administraciones que tienen competencias en la materia que comparte y colabora con ellos por tanto cuidar esa interlocución con las instituciones es una de las tareas que ejerce esta sección pero además hay una labor importante de asesoramiento y colaboración especializada con las propias unidades de las comisarías de la ertzaintza para que toda la organización actúe con criterios homogéneos

específica que tiene esta sección hay que destacar la labor que despliegan en cuanto a la formación a través de la propia academia vasca de policía y emergencias han contribuido con resultados muy positivos a la formación de

que realizan patrullas rurales la formación de las nuevas formación específica también en temas medioambientales para los cursos de ascenso a oficiales y agentes primeros tengo que decirle que a lo largo de dos mil dieciséis se desarrollaron un total de doce ediciones formativas en temas medioambientales de las que participaron

de la planificación para dos mil diecisiete están previstas otras veintiuno ediciones

lógicamente que la labor nuclear la realiza la sección de medio ambiente y urbanismo y la labor nuclear es la de investigación de los delitos que se cometen

siempre como digo en estrecha colaboración con las fiscalías territoriales y esta es la realidad actual el trabajo diario que realiza esta sección central de delitos contra

como digo un grupo que se ha consolidado a lo largo de estos años eskerrik asko

le agradezco las explicaciones señora beltrán de heredia pero

no es tan alentadora digamos respecto a los medios humanos el grupo tiene siete personas desde que se creó en dos mil nueve

debido al cese de la violencia en euskadi y a pesar de que el grupo que tenían los miñones sobre medio ambiente fue desmantelado también aun así no se ha aumentado en ninguna persona más el grupo desde sus inicios

el grupo tiene un vehículo para desplazarse un medidor para gases tóxicos que les regaló la fiscalía de medio ambiente de madrid y un maletín para investigar incendios forestales

en estos años la única formación que recibieron fue un curso de investigación de incendios nada más

esa ausencia de formación hizo que en dos mil catorce la propia fiscalía en su memoria

se obtuvo como solución que siguiera siendo ura quien tomara las muestras correspondientes en casos de vertido y esto me hace llegar

tan solo está colaborando con ura para la toma de esas muestras de vertidos y con la sociedad de ciencias aranzadi cada vez que los agentes toman una muestra de agua la están llevando

yo me pregunto no hay ningún laboratorio oficial en todas las administraciones vascas sean del departamento de sanidad consorcios de aguas

y se ayuden mutuamente aunque sea por medio de convenios dónde está la obligación constitucional de colaborar con la justicia qué ha hecho el departamento o la propia dirección de la ertzaintza para optimizar los recursos humanos especializados de los que disponen las distintas administraciones vascas sean agentes forestales inspectoras de medio ambiente o técnicos de investigación de incendios en los bomberos creemos que hoy en día la situación de este grupo dedicado a delitos medioambientales es un reflejo fiel de la situación en la que se encuentra la propia ertzaintza

alguna explicación que nos evite pensar que en realidad la dirección del departamento lo que busca deliberadamente es que no se investiguen los delitos contra el medio ambiente porque convendríamos que eso es un tema

para que también en estos ámbitos se cumpla lo que establece la ley tienen un conocimiento detallado de cuáles son las competencias de cuál es el reparto

por tanto en la relación con los responsables de las distintas instituciones no solamente es continuo sino que

esta relación de colaboración se extiende también a los órganos judiciales que están dedicados a la persecución de este tipo de delitos no en vano

el reconocimiento y la estima profesional que tienen al grupo a la sección de medio ambiente y urbanismo de la

colaboran sabe usted estrechamente con las fiscalías provinciales

por ejemplo en la campaña anual de prevención de incendios se trata por tanto de una sección que está consolidada que está estructurada que está formada
y que está en constante actualización y que colabora permanentemente con todas las instituciones que son competentes eskerrik asko

gracias señora presidenta lehendakari consejeros y consejeras

hace unos días tuvimos conocimiento de la campaña sobre seguridad laboral que tenía previsto desarrollar el departamento de trabajo y justicia a través del organismo autónomo osalan

el lanzamiento de la campaña con la celebración del día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo que por iniciativa de la organización internacional del trabajo

desde el año dos mil tres decía que me parece muy acertadas las fechas elegidas pues el fin de celebración instaurada por la oit

profesionales en todos los países del mundo coincido con ustedes en la importancia que tiene la prevención para minimizar al máximo la siniestralidad laboral y también comparto que para prevenir la información es clave es absolutamente fundamental que los trabajadores y trabajadoras tomen conciencia de que el accidente laboral no es algo irremediable me parece fundamental

que contribuyan a la incorporación de conductas seguras y saludables en el trabajo por otra parte trabajo y salud son conceptos perfectamente compatibles

un deber de los empresarios hacia los trabajadores y trabajadoras es importante conseguir su identificación

en un rasgo característico de la sociedad vasca para ello

la toma de conciencia por parte de los trabajadores y trabajadoras la implicación de sus representantes

la responsabilidad y compromiso de las empresarias y los empresarios en esta tarea ya que en última instancia son ellos quienes tienen que velar

evaluar sus riesgos y realizar la planificación preventiva con el fin de prevenir la siniestralidad laboral quiero reiterarles señora consejera

con la iniciativa de su departamento con el fin que persigue y esperemos que los resultados sean los marcados

estaremos contribuyendo a mejorar la seguridad y la salud laboral de nuestra población trabajadora pero dada la importancia de esta campaña la oportunidad de la misma el colectivo al que va y la repercusión social que está teniendo quisiera que hoy nos explicase más pormenorizadamente el fin el alcance los contenidos y los medios que se están utilizando en su desarrollo por eso le formulo la siguiente pregunta cuál es el contenido de la campaña

en un asunto tan importante como es la necesidad de actuar con todos los medios a nuestro alcance para prevenir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales en el gobierno vasco nos hemos marcado como prioridad reducir las tasas de paro por debajo del diez por ciento

porque tanto el empleo existente como el que se cree sea de calidad quiero manifestarle rotundamente que para conseguir que el trabajo sea de calidad una característica fundamental

trabajo de calidad trabajo seguro es un binomio inseparable conseguirlo es una exigencia a la que tenemos que responder todos los que tenemos alguna responsabilidad al respecto en el departamento de trabajo y justicia estamos empeñados en conseguir que nuestros trabajadores y trabajadoras cuando vuelvan a su casa después de una jornada laboral lo hagan en las mismas condiciones

queremos desterrar la idea de que el accidente laboral o la enfermedad profesional son inevitables o inherentes al trabajo

materiales y normativos uno de nuestros instrumentos fundamentales es el organismo autónomo osalan instituto vasco de seguridad y salud laborales que cuenta

actúan en el ámbito de la seguridad y la salud laborales sus profesionales son requeridos desde muy diferentes lugares para que comuniquen su experiencia y buenas prácticas

adquieran la formación adecuada es importante la labor que realizan los y las profesionales de osalan para recopilar y ordenador datos y estadísticas que están permitiendo analizar la evolución de las condiciones de trabajo

es por otra parte fundamental la función inspectora para corregir prácticas y comportamientos no adecuados en los centros de trabajo en relación con la seguridad y la salud

estas y otras funciones contamos con nuestros medios pero también requerimos la colaboración de los agentes sociales y la implicación como

toda esta experiencia y trabajo están dando resultados hoy la sensibilización social hacia la necesidad de preservar la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras es mucho mayor que hace unos años

no podemos darnos por satisfechos nunca porque siempre se podrá hacer algo más por nuestra parte queremos llegar

a que todos los trabajadores y trabajadoras vascas tengan información y se sensibilicen de la importancia de la seguridad y salud laboral aspiramos a impregnar a toda la sociedad vasca de la necesidad de adquirir conductas seguras y saludables para llegar como he dicho hasta el último trabajador

que la seguridad laboral forme parte de tu vida egizu lan segurtasuna zure bizitzaren parte

señorías este es el contenido alcance y filosofía de la campaña emprendida siempre teniendo en cuenta que el trabajo de calidad es trabajo seguro eskerrik asko

gracias señora presidenta señor lehendakari señorías muy buenos días a todos

la satisfacción que comparto con usted por la posibilidad de entendimiento

esta semana así que no va a ser una pregunta muy incómoda

la importancia que tiene lo que es el mismo acuerdo de presupuestos en el acuerdo cerrado con su grupo parlamentario y el de mi partido en madrid que yo creo que es particularmente beneficioso para el país vasco en la medida en que garantiza unos compromisos de inversión

en euskadi y también mejora la competitividad de nuestras empresas y por tanto nos da una opción para seguir un trabajo de recuperación en euskadi que llegue a la gente que llegue a la gente en términos de empleo

y también un acuerdo importantísimo que yo creo que viene a cerrar una disputa que duraba ya una década y que también ofrece tranquilidad para poder trabajar en el futuro y que el señor erkoreka decía la paz fiscal durante quince años pero realmente son acuerdos que tienen calado y que son importantes en el discurso de investidura yo se lo dije y le dije que si usted optaba por ese camino y

y la creación de empleo no estaría solo y que las diferencias las dificultades y los conflictos que mantenía el gobierno vasco con el gobierno de españa la diferencia y la dificultad de interlocución entre nuestras dos formaciones políticas podía ser sustituida por una relación distinta lo hemos hecho se ha venido trabajando a lo largo de los meses y creo que el fruto es muy positivo para el conjunto

yo sé que usted no tiene un carácter que le tire hacia la radicalidad y espero que eso también sea garantía de que este comportamiento y esta voluntad de diálogo

da lugar a estos éxitos pues se pueda extender y me parece muy necesario que se extienda y que ahora que hay un momento de recuperación económica y que las cosas pueden ir bien demos esa necesaria garantía de estabilidad

no ya en el acuerdo puntual este año de unos presupuestos aquí en el país vasco o en madrid sino para tener un horizonte despejado de trabajo para que el gobierno pueda hacer y para que la recuperación llegue de verdad al conjunto de los ciudadanos vascos en términos de oportunidades de empleo en términos de mejora de las condiciones de sus empleos en términos también de garantía

yo me hago una reflexión viendo lo que ocurre en el país vasco

ya no es que el eje político haya cambiado nacionalistas no nacionalistas o de

de moderación y radicalidad de razón y populismo

lo que se está debatiendo y lo que se dirime también en francia este fin de semana en ese eje y en esa discusión y en ese dilema que ha traído la crisis nosotros vamos a estar siempre del lado de la moderación y vamos a estar

por último yo le quiero pedir que sean responsables y prudentes a la hora de vender el acuerdo es muy legítimo que su partido saque pecho pero tengamos cuidado

que tienen prejuicio hacia las libertades de los vascos para dañarlo y por tanto seamos prudentes expliquemos que efectivamente esto garantiza la solidaridad de los vascos con el resto

que sea responsable y que ayude también a defender el concierto económico las virtudes que tiene

no creo que se trate del carácter de cada uno creo que se trata más bien de la voluntad de llegar a acuerdos pero en cualquier caso

e institucional es permanente no de ahora es permanente y lo va a seguir siendo yo valoro la estabilidad al servicio del crecimiento económico y de la creación de empleo

de la anterior legislatura usted decía aprovechar estos años

nosotros como gobierno vasco ya en la anterior legislatura también abogábamos por la estabilidad basada en los acuerdos conscientes de nuestra posición de minoría entendimos que la estabilidad política e institucional era imprescindible también en la legislatura pasada

y el acuerdo por convicción acordamos por ejemplo en septiembre del año dos mil trece un programa marco de empleo y de reactivación económica con el partido socialista

amplio consenso institucional también con su partido acordamos también con el partido popular por lo tanto en la legislatura pasada como acordamos con instituciones gobernadas por otras formaciones políticas como es el caso de bildu en la diputación foral de gipuzkoa y estos acuerdos han tenido su traslación al conjunto institucional de euskadi y este es también

de la coalición de gobierno entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi en esta legislatura en esta senda reconocemos los acuerdos que nos han permitido aprobar

como también el nuevo programa marco de empleo y de reactivación económica nosotros creemos en un modelo de estrategia compartida de colaboración institucional y de colaboración público privada también el tejido económico nos está demandando y colaboración y esta colaboración de la que resulta la estabilidad ha permitido aprobar los presupuestos ha permitido también en referencia a lo que usted explicaba sentar las bases para la liquidación del cupo y la actualización del concierto

son pasos positivos en la buena dirección hoy euskadi crece y se crea empleo hace cuatro años había cuarenta mil personas que estaban en la cola de lanbide y hoy están trabajando

del diálogo y el acuerdo porque todavía tenemos mucho empleo por crear en euskadi creemos por lo tanto en el acuerdo y en la colaboración

no desde la necesidad sino desde la convicción es evidente que coincidimos en que la estabilidad política es condición necesaria para el crecimiento y para la creación de empleo

insisto como fruto del diálogo y la negociación entre diferentes para buscar puntos de encuentro en común y esto es lo que dota de solidez a la estabilidad

confianza en el mundo de la empresa para la inversión para el crecimiento para el empleo

relevante es que cuatro años después se ha abierto una puerta al diálogo y la negociación entre el gobierno vasco y el gobierno español una puerta abierta de la que resulta también un escenario de estabilidad y mi deseo

sin falsos orgullos es que esa puerta se haya abierto con convicción porque son

ez da soilik aurrekontu batzuk onartzea esa contrapartida supone apuntalar el resquebrajado reino de españa

que hace aguas por todas partes eta hori apuntalatu duzue zuek ezarritako puntal horiekin

no vaya a ser que el tema de nacho nos pringue a todos hori da

egin duzuena ha sido darle un tiro en el pie a cataluña

que no solamente en el estado español el acuerdo alcanzado suscita críticas también aquí en euskadi el acuerdo suscita críticas nuestro objetivo es defender los intereses de euskadi desde el gobierno vasco y lo hacemos aprobando en un tiempo récord los presupuestos de euskadi

aprobados sin cerrar la puerta a ningún partido tampoco el suyo

aprobados desde luego con intención y el compromiso de cumplir lo acordado en su integridad nuestro objetivo es defender los intereses de euskadi lo mejor para euskadi

es nuestra responsabilidad durante diez largos años desde dos mil siete todos los gobiernos han intentado alcanzar un acuerdo sobre el cupo

ahora sí es posible y usted pretende que no firmemos un acuerdo que es positivo para euskadi nadie lo entendería menos cuando la propuesta parte de usted le recuerdo algo que usted parece querer olvidar hace poco más de tres años enero de dos mil catorce

bildu era el partido que gobernaba la diputación foral de gipuzkoa usted era diputada y portavoz de esa diputación

del gobierno español y del partido popular me puede explicar por qué en aquel momento usted sí se podía reunir dialogar y acordar con el gobierno español del partido popular y ahora no se puede hacer nuestro objetivo es hoy el mismo de hace tres años y es transparente señora ugarte solventar las liquidaciones del cupo pendientes

tomar el año dos mil diecisiete como año base para lo que pueda ser la nueva ley quinquenal aprobar esa ley quinquenal dos mil diecisiete dos mil veintiuno y actualizar

estos mismos eran los objetivos de la diputación foral de gipuzkoa cuando usted era diputada y portavoz eran y siguen siendo los objetivos del gobierno vasco las negociaciones entonces y ahora con el gobierno español del partido popular el mismo entonces

me gustaría que me dijera usted con qué objetivos planteados no está usted de acuerdo y por qué

de forma que puedan crear más empleo garantizar las inversiones para la llegada de la alta velocidad a euskadi el soterramiento de la entrada a las capitales

realización de las obras hidráulicas de saneamiento del alto nervión gestión de los terrenos que ocupa la central nuclear de lemoiz garantizar las tasas de reposición de la ertzaintza para facilitar la renovación generacional flexibilizar las tasas de reposición en los servicios básicos de forma que se pueda ampliar las ofertas de públicas de empleo especialmente en salud y educación horiek dira gure helburuak ugarte andrea

eta sinatutakoa betetzea soy el primero en exigir que cualquier persona o partido político debe responder ante la justicia ante cualquier caso de corrupción y esa será su penitencia

también la que le corresponde a bildu por su gestión en la diputación foral de gipuzkoa y también les exijo a ustedes coherencia

este año ustedes eh bildu ha aprobado en comisión el setenta y cinco por ciento de las enmiendas presentadas

eh bildu ha votado tres de cada cuatro veces con el partido popular me recriminan que hable y negocie con el partido popular

y ahora dice que no es que hable y negocie no sino a cambio de qué

hablar y negociar con el partido popular supuestamente corrupto pero al mismo tiempo me apelan para que negocie una nueva política penitenciaria con el gobierno español del partido popular son muy estrictos con los criterios éticos que exigen a los demás pero durante años y años ustedes han mantenido una posición diré

lo dejo ahí nada ética en relación con el terrorismo son capaces de acusar de corrupción al partido nacionalista vasco o al partido socialista de euskadi incluso por la mañana

y también me voy a quedar en un término más eufemístico que el que me viene en estos momentos a la boca

que yo pude utilizar en una expresión no en mi intervención inicial sino en respuesta a unas preguntas

antes se debe aprobar en las juntas generales de los tres territorios históricos antes se debe alcanzar un consenso sobre unas propuestas que han de ser previamente presentadas

antes debemos compartir un análisis y evaluación de los resultados de la reforma durante estos tres últimos años así como de la situación y de las perspectivas de la economía las necesidades financieras de las instituciones para cumplir sus compromisos

hoy es cinco de mayo y la entrada en vigor debe ser el uno de enero del dos mil dieciocho

señor lehendakari la verdad es que lo que las últimas palabras de los diputados de hacienda nos han hecho ver es que una vez más esto se va quedar en agua de borrajas una vez más la tan

quitamos un par de cositas y ya está y lamentablemente eso no es lo que decía el señor azpiazu o por lo menos señor azpiazu no es lo que usted trasladó

había todavía opciones de subir la presión fiscal y que había opciones

lo que están trasladando a las diputaciones es que es poco movimiento

es que va a seguir la senda marcada por el partido popular en política fiscal

que poquito movimiento si realmente quiere hacer una reforma fiscal nos tendrá de compañeros de camino

la reforma fiscal antes de que nazca porque eso es lo que están diciendo las diputaciones que no van a hacer esa reforma fiscal lo que van a hacer es un apaño un apaño para alegrar para contentar a los nuevos compañeros que se han buscado ustedes que es el partido popular

porque el partido popular no tiene ningún interés en que en este país tengamos suficiente dinero para que los servicios públicos sean los que este país se merece y para que la sociedad vasca avance

bat gatoz eta horrela dio sinatu dugun gobernu programak estamos dando por lo tanto estricto cumplimiento al programa de gobierno que dice

la actualización de la normativa fiscal precisa para incentivar la actividad económica la innovación y el empleo y para salvaguardar las políticas sociales

desde la consecución del más amplio consenso institucional y político posible este es nuestro compromiso compartido en el órgano de coordinación tributaria eskerrik asko

el relator especial de naciones unidas para los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo martin scheinin

y en su informe posterior decía el marco legislativo español para la lucha contra el terrorismo se ha elaborado en función de la lucha contra eta

mostraba su preocupación por las medidas que se ponen en marcha cuando un delito se califica de terrorismo y enumeraba esas medidas se hablaba de la detención incomunicada la competencia exclusiva de la audiencia nacional la posibilidad de mantener a los sospechosos de terrorismo en prisión provisional con un periodo de hasta cuatro años

de la modificación de las normas relativas al cumplimiento de las penas denunciaba por lo tanto que españa se estaba precipitando por una pendiente resbaladiza y la explicaba la ampliación

grave contra los ciudadanos hau orain dela hamar urte

propuestas para abandonar la situación de excepcionalidad y volver a la normalidad abogamos por la modificación de la ley orgánica siete barra dos mil tres y saben ustedes como sabemos nosotros que aquí está

en lo que es la modificación de la ley orgánica siete barra dos mil tres dado que el uso de la violencia y de su amenaza han desaparecido de manera fehaciente y definitiva

abogamos por buscar el máximo acuerdo para aplicar las recomendaciones expresas que vienen realizando tanto instituciones como organismos internacionales de derechos humanos

egun on berriz señora beltrán de heredia durante los pasados meses le he formulado algunas preguntas respecto a las pistolas eléctricas táser que adquirió su departamento para el uso por parte de la brigada móvil de la ertzaintza las que ahora son las patrullas de respuesta inmediata

diversas afecciones de salud como personas con marcapasos con cardiopatías graves epilépticas asmáticas o con síndrome de sensibilidad electromagnética por decir entre otras

la verdad es que la falta de respuestas concretas me ha sorprendido de ahí que haya decidido a interpelarle a usted acerca

y considero que estas garantías tienen que ver con dos cuestiones principales por un lado la seguridad o la inocuidad de las propias pistolas y por otro lado cómo cuándo y dónde van a ser utilizadas dichas pistolas por los agentes es decir cuál va a ser el protocolo de actuación

yo le planteé esta cuestión porque imagino que usted conoce que

al uso de pistolas taser en estados unidos en un plazo de tiempo de tan solo diez años de esas quinientos muertes según amnistía internacional y leo textualmente los forenses citan las armas taser como causa o factor contribuyente de más de sesenta fallecimientos los forenses no amnistía internacional

el riesgo es mayor en personas que sufren enfermedades cardíacas o cuyos organismos corren más riesgos debido a una intoxicación por drogas o

y aquí tengo que decir que amnistía internacional en su informe de dos mil doce mencionaba que entre los quinientos casos analizados textualmente dice el noventa por ciento de los fallecidos

decía que en una de sus respuestas que nos entregaron ustedes desde el departamento indicaban que taser están homologadas por el fabricante para el uso que se va a realizar de las mismas existiendo los certificados correspondientes sin embargo cuando les pedí esos certificados de homologación resultó que no existían o en la siguiente respuesta dijeron que no existían en su lugar me hicieron llegar un informe un informe técnico

confidencial pone aquí aunque ustedes se lo han hecho llegar ayer a la prensa en el que la empresa fabricante aporta unas explicaciones médico científicas acerca de la bondad de las descargas eléctricas pero y esto es lo que quisiera resaltar aquí la empresa fabricante certifica o se responsabiliza de que las armas sean seguras en su uso contra cualquier tipo de persona y en cualquier circunstancia y quiero resaltar la palabra cualquier porque en ese informe se habla concretamente de los marcapasos pero no se dice nada de las personas epilépticas de las asmáticas o personas que tengan cardiopatías previas

en caso de que las armas no sean tan seguras como dice la responsabilidad última recaerá siempre en el departamento el departamento o en los

en mi primera pregunta por escrito solicité una copia del protocolo de utilización de estas armas y la verdad es que todavía lo estoy esperando a la prensa sí se le ha dicho que lo hay y yo imagino que

un suceso luctuoso en el que se vean involucradas estas armas

ya se ha visto lo sucedido en el caso cabacas donde la responsabilidad penal siempre siempre

en las informaciones de prensa de hoy fuentes del departamento dicen y cito textualmente que los agentes deciden

cómo reaccionar y los medios a emplear claro de ahí la importancia de que exista un protocolo serio riguroso y consensuado con los y las propios agentes que deben utilizar esas armas que recoja todas las posibles situaciones inseguras que se pueden dar en el uso de las pistolas eléctricas y citaré tres condiciones

la primera es que las pistolas taser provocan una descarga eléctrica hacia el individuo sospechoso que provoca que este pierda el control de sus brazos y piernas durante al menos cinco segundos

un atropello en la vía pública o cualquier otro percance indeseado por ejemplo las caídas también pueden ser fatales si se usan contra mujeres embarazadas

pero quién sería el responsable en este caso pues evidentemente los y las agentes de a pie

por otra parte el taser es un equipo eléctrico y como tal su uso en ciertos recintos puede provocar la explosión de líquidos o vapores inflamables como gasolina gas natural alcohol

corre peligro al emplear esas armas en esos lugares en función de dónde se vayan a utilizar y la tercera circunstancia especial que hace inútiles a las pistolas taser es el hecho de que la persona

la pistola lanza dos dardos que se clavan en la piel y a continuación llega la descarga

es decir que posiblemente no funcione con aquellas personas que realmente vayan equipadas para hacer daño de verdad porque de lo que yo sé

y esto me lleva a hacer una última reflexión que creo que es pertinente en el informe dice textualmente en la página quince no nos dejemos engañar es una garantía de buen uso que el taser solo pueda ser utilizado por la policía siempre y cuando esta lo haga de manera adecuada y es que el uso adecuado no solo tiene que ver con el cómo cuándo y el dónde al que me acabo de referir sino que también tiene que ver con la proporcionalidad en su uso y esto tiene que quedar muy claro en el protocolo de actuación porque

parece que diera implícitamente carta blanca para utilizarla con mayor asiduidad y con menores prevenciones

se utiliza el arma reglamentaria tengo que decir aquí que amnistía internacional en su informe de dos mil doce mencionaba que entre los

textualmente dice el noventa por ciento de los fallecidos eran personas desarmadas y dice también textualmente que muchas de las víctimas fueron objeto de múltiples descargas

sino que se produjo un ensañamiento por el mero hecho de que como o era un arma letal

eso tuvo unas consecuencias nefastas concluía amnistía internacional con una sentencia

a la proporcionalidad en el uso de las armas de este tipo al igual que cuando se utilizan otros materiales como las propias pelotas de goma dice así amnistía internacional lo más inquietante sobre el uso por la policía de las armas taser es que la mayoría de las personas que posteriormente murieron no representaban una amenaza grave cuando la policía les sometió a las descargas

antes de poner en la calle unas armas como las que nos estamos refiriendo hoy mejor prevenir

egun on berriro en primer lugar efectivamente recordarle señor becerra que estos dispositivos estos dispositivos electrónicos las

mes de marzo se acaban de incorporar efectivamente como un mecanismo más de la dotación policial para uso exclusivo

móvil y en concreto como bien ha dicho usted para las patrullas inmediata patrullas que están operativas desde el mes de diciembre patrullas que a diferencia de los de seguridad ciudadana están compuestas por tres miembros un oficial

que han recibido formación e instrucción específica

instrucción específica también para el uso de estas armas instrucción para atender e intervenir en aquellos incidentes en los que la actuación de las patrullas de seguridad ciudadana se considere insuficiente

por su peligrosidad estas patrullas de seguridad ciudadana necesitan verse

reforzadas por agentes más cualificados con un adiestramiento propio con adiestramiento específico con una dotación de material técnico y operativo a la situación que han de controlar son patrullas de respuesta inmediata que van a atender e intervenir en situaciones de riesgo elevado de riesgo grave para la seguridad de las personas o de los bienes y es en ese contexto en ese contexto

otras policías del mundo ha visto conveniente contar con estos mecanismos estos dispositivos electrónicos de control conocidas como le decía antes como

y como procede siempre a la hora de adquirir nuevos materiales como se procede siempre

se toma en consideración y se analiza exhaustivamente por una parte

las indicaciones y las especificaciones técnicas de homologación y las exigencias de control de calidad del propio fabricante en este caso y en todos los demás también se analizan las experiencias contrastadas que tienen otros cuerpos policiales que ya vienen haciendo uso de estos mecanismos de control y sobre todo insisto sobre todo se tiene en cuenta la valoración y la validación de las muchas muchas pruebas que han realizado ya personal

y es así como este personal experto y óomo los responsables policiales

deciden el procedimiento de utilización de estos dispositivos electrónicos acotando exclusivamente su uso a personal móvil y más concretamente al personal que está destinado en las patrullas de respuesta inmediata en todo caso como digo para ser utilizadas en situaciones excepcionales debidamente evaluadas en aquellos incidentes en los que

a las personas extremadamente agresoras solo con técnicas de defensa personal para garantizar mejor la seguridad de esa persona agresora de los propios agentes y de terceras personas que pudieran verse afectadas evidentemente la incorporación o la decisión de la incorporación de estas armas

por supuesto como le he dicho antes de la necesaria formación en el uso que requieren

que puede llegar a utilizarlas ha recibido formación específica para que llegado el caso llegado el caso en el que tengan que usarlas estén debidamente instruidos y es personal autorizado para su uso

perfectamente delimitado el ámbito de utilización fijados los procedimientos de uso formados los agentes que tienen que usarlos por tanto usted no las va a ver en patrullas de seguridad ciudadana

o en su caso los grupos de intervención y si en algún momento fuera testigo de una

pues verá que la utilización la hace un operador autorizado de taser

en cualquier caso siempre se va a tratar de una actuación policial en la que los responsables tengan que hacer frente

que hayan considerado y evaluado sobre el terreno efectivamente evaluado sobre el terreno la necesidad de utilización de este dispositivo electrónico

o como alternativa al uso del arma de fuego reglamentaria como ya conoce usted estas pistolas paralizantes como cualquier otra

está regulada por el real decreto ciento treinta y siete barra noventa y tres que fue revisado en el dos mil once y que establece el reglamento de armas

a los funcionarios específicamente habilitados por tanto

militares están incorporadas en muchas policías europeas y no europeas y es cada departamento de seguridad cada responsable

a las circunstancias que considera para que se haga una idea en el estado

por cierto algunos de los municipios gobernados por ustedes evidentemente

y adaptados a las circunstancias de cada cual yo puedo venir y responder por lo que

en nuestro caso como digo aprobados limitado el uso a la brigada móvil en el caso concreto a patrullas de intervención y como siempre el uso

por la evaluación que haga el agente en la situación concreta en cualquier caso

una manifestación un empleo de la fuerza y por tanto tiene que estar sujeto a los criterios y a los estipulados que vienen observándose para el uso de la fuerza y que rigen el uso de la fuerza y cuando hablo de principios estoy hablando del principio de legalidad que debe regir cualquier actuación policial y de respeto

que se ajuste al principio de excepcionalidad lo que implica que se han agotado otros recursos menos lesivos o la imposibilidad del uso de esos otros recursos y que respete el criterio de proporcionalidad lo que recuerda que la fuerza empleada siempre tiene que ser

a la fuerza agresora que lo motiva y que se ajuste al

es decir que responda por tanto a una valoración previa de riesgos antes de actuar siempre hay que valorar esas circunstancias que rodean el hecho

hay que valorar los riesgos que existen para la persona agresora para los propios agentes para terceras personas para los bienes y en cualquier caso hay que procurar siempre actuar causando la menos lesividad posible que es el criterio con el que actúa siempre la

las precauciones que son habituales en este tipo de armas y que se recogen a través de las instrucciones policiales por cierto ustedes la pregunta pidiendo el procedimiento la hizo el ocho

las pistolas taser no estaban distribuidas y el procedimiento no estaba concluido y en este caso le decía las precauciones y las formas de uso

de utilización del dispositivo electrónico de control taser y que entró en vigor como le digo cuando se distribuyen estas pistolas

por tanto dispositivos homologados uso restringido

inmediata valoración de la situación en las que hay que utilizarlas y siempre siempre como

otros medios menos lesivos y como alternativa al uso de las armas de fuego existe un procedimiento perfectamente delimitado y que determina igual que para el resto de las armas cuándo

respecto a las dos cuestiones que le planteé al principio la referente a la propia seguridad de las armas

me parece una cuestión fundamental porque

y tengo que recordarle el caso de juan calvo detenido por la ertzaintza en agosto del noventa y tres y que según la sentencia judicial condenatoria falleció en una celda de arkaute debido al gas usado por los agentes para reducirle lo que le provocó el edema pulmonar que le mató

no había advertido de los riesgos asociados se lo quiero decir porque

no lo certifica con lo cual me reitero en esta cuestión que es el departamento de seguridad quien va a asumir toda la responsabilidad en el caso de que haya

claro porque usted me ha dicho bueno efectivamente se van a utilizar en unas condiciones con una valoración de riesgos y es cierto que muchas veces la ertzaintza se tiene que enfrentar a personas con una agresividad extrema posiblemente porque hayan consumido estupefacientes o hayan salido de una pelea

pero precisamente es el propio fabricante el que dice que es en esos casos donde hay riesgo de muerte súbita cuando se utilizan con las personas que están en un estado de excitación extraordinaria entonces

que dentro del protocolo cuando se deja a los agentes de a pie la posibilidad

corpulenta agresiva en unas condiciones de exaltación extraordinarias pues que obviamente como le han dicho que no es un arma letal

tome la decisión de utilizar esa pistola pero es precisamente en esas condiciones

y existen otras armas como las porras extensibles que permiten reducir a ese tipo de personas sin necesidad de utilizar armas de este tipo que como digo están puestas en cuestión

porque usted ha dicho que hay que causar la menor lesividad posible pues eso también implica utilizar las armas adecuadas y yo creo que se debería evaluar mejor la cuestión de las armas taser porque

pero si hay quinientos casos ya de muertes donde se han visto involucradas las pistolas pues yo creo que habría que actuar con una cierta prudencia y bueno

yo lo que sí le pediría es que ese procedimiento fuera consensuado con los y las agentes de a pie que lo tienen que utilizar con su representación sindical o con quien corresponda porque como digo

que la responsabilidad le va a corresponder al departamento pero la responsabilidad penal le va a tocar

que tome la decisión de utilizar esa pistola en un momento determinado

sean esos y esas agentes quienes en última instancia conozcan el procedimiento hayan dado el visto bueno al procedimiento y de alguna manera haya un consenso para que cuando luego

vengan mal dadas pues evidentemente no se lave todo el mundo las manos y acaben imputadas las agentes que al final están en la calle que son quienes sufren el riesgo y quienes en un momento dado en respuesta a ese riesgo

armas las armas son seguras si no se utilizan son seguras si no se utilizan siempre depende del uso y de la forma en la que se utilicen lo mismo que un vehículo cuántas muertes hay por cuestiones derivadas de tráfico un vehículo es seguro

luego riesgos el riesgo siempre existe la seguridad cien por ciento nunca

y existen infinidad de informes técnicos médicos periciales forenses policiales que hablan del alcance de las pistolas taser en cuanto a sus efectos secundarios y en especial sobre sus efectos sobre la salud pero en cualquier caso ese

y periciales que es lo que ha permitido su homologación y que están permitiendo el uso regulado en manos de funcionarios públicos de los cuerpos policiales

debidamente formados y adiestrados se trata por tanto de un instrumento de uso policial que se sitúa entre las armas de fuego y las técnicas de defensa

y que podrían tener consecuencias más graves de utilizarse armas de fuego por tanto es una alternativa evidentemente hay que evitar el uso siempre que se pueda y siempre que sea posible y ese es un principio que tienen claro todos y cada uno de los y de las agentes

su manejo pero ese principio elemental básico tampoco

a situaciones concretas para garantizar la seguridad de las personas y evitar males mayores desde luego no ponga

la incorporación de estos dispositivos taser a las patrullas de respuesta inmediata y tampoco ponga en duda buen hacer profesional de los instructores de los agentes que están específicamente formados para afrontar esta responsabilidad los procedimientos son claros

la instrucción que están dando los profesionales es la que han considerado la más adecuada y necesaria son profesionales de la seguridad pública son

garantes de nuestra seguridad debidamente formados y debidamente adiestrados

sea más o menos lesiva siempre siempre tiene que ser excepcional porque excepcional va a ser también la situación en la que se ven obligados a utilizarlas o situaciones excepcionales en las que obligados a resolver respondiendo a la pregunta que daba origen a esta interpelación si la incorporación de estos dispositivos electrónicos de control de la ertzaintza estaban homologados le tengo que decir que

de evaluación y de validación que están establecidos se han establecido en detalle los procedimientos y las precauciones de uso que hay que adoptar

con mucha precisión los ámbitos de utilización y también las responsabilidades que conlleva su uso se han definido los controles de uso y las medidas de precaución

afectada sufra daños innecesarios incluso una vez que ha sido controlada la situación para todo ello y sobre todo

al personal que está habilitado para su utilización en base a la normativa que es aplicable en base a los principios generales establecidos en el ertzaintza sobre el uso

es decir respeto a los criterios que rigen en la utilización de la fuerza y desde luego alternativa para cuando se hayan agotado recursos menos lesivos alternativa al uso de las armas no podemos garantizar que nunca vaya a suceder nada de la misma manera

que dependiendo del uso que se haga de un vehículo vaya a haber un fallecimiento por causa de uso de ese vehículo como le digo la garantía la seguridad cien por ciento

no existe los riesgos están ahí tenemos que asumirlos y eso es parte de nuestra responsabilidad la responsabilidad es hacer un uso ordenado y un uso consecuente de cada uno

señora pinedo una matización a la manera en que se ha formulado la pregunta ya que la ley de instituciones locales de euskadi no encomienda al gobierno

que como sabe es un órgano mixto compuesto en este momento por el gobierno las diputaciones

amaitu baina horretan dago dicho esto lo cierto es que el grupo de trabajo interinstitucional creado en el seno del consejo vasco de finanzas

y financiación que demanda la ley de instituciones locales aún no ha concluido sus trabajos

de presupuestos el día veinte de enero pasado anuncié que el grupo creado

lo antes posible desde entonces el grupo además de constituirse ha celebrado tres reuniones

y el diez de marzo y en ellas se ha establecido una metodología de trabajo un contenido de índice de informe y la identificación de la documentación necesaria

la información recopilada y llegar a unas conclusiones y en eso se está precisamente ello no resulta tarea fácil como es entendible

tres niveles institucionales en un modelo financiero y competencial recién estrenado con casi toda probabilidad este mes habrá nuevas reuniones para seguir avanzando el objeto

es conseguir una buena ley de aportaciones y me comprometo a cerrarlo cuanto antes de forma que redactemos la nueva ley este mismo año

tomaron esa responsabilidad y la realidad ha sido que hasta febrero como bien usted ha indicado no se ha dado el primer paso es decir diez meses diez meses que se han perdido diez meses que se han perdido en una cuestión que es primordial primordial para la financiación de las entidades locales de nuestro país porque lo venían reclamando

una reclamación porque se haya hecho la ley diez meses que se podían haber hecho muchas cosas y lamentablemente no se han hecho nos alegramos de que se hayan hecho tres reuniones teníamos bueno

información pero la verdad es que es una cuestión fundamental como usted bien ha dicho porque hay que aprobar una nueva ley de aportaciones

que habrá que aprobar más pronto que tarde como decía aquel

ese modelo por mucho que usted me diga que no es una tarea fácil incorporar tres niveles institucionales

optó no es el que ha optado esta parlamentaria por lo tanto pues bueno pero insisto es un incumplimiento

y estamos a cinco de mayo si era tan urgente la ley de aportaciones creo que no hubiera pasado nada

más de velocidad a la hora de formar un grupo a la hora de empezar a trabajar para algo que se tomó

los representantes del gobierno vasco en el consejo vasco de finanzas que se decidió en la negociación de la propia ley que usted bien sabe

que los municipios las entidades locales del país tienen una necesidad de aclarar cuál es su modelo de financiación
porque nos lo vienen reclamando históricamente y porque nos lo siguen reclamando eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea

el ritmo y el trabajo depende del conjunto de instituciones no solo del gobierno vasco y este gobierno apenas lleva cinco meses de funcionamiento la ley es muy anterior pero hubo trabajos ha empezado a marchar

y créame que nadie está más interesado desde luego que el gobierno en culminar el análisis y el estudio

no lo veo útil simplemente para asegurar una instrucción adecuada del gasto público en la administración vasca tal y como dice textualmente la ley

y que ha recordado usted al formular la pregunta sino sobre todo porque este país y su conjunto institucional

de funcionalidad y con el consenso de todas las instituciones antepongo un informe sosegado y consensuado

para elaborar una buena y duradera ley de aportaciones

el mandato de este parlamento en cuanto al plazo en cualquier caso desde el gobierno vasco consideramos

diseñar una ley de fondo fundamentada en el consenso institucional y esto es importante el consenso y que garantice la suficiencia financiera

señor erkoreka buenos días durante la profunda y grave crisis económica por la que hemos atravesado a lo largo de los últimos años de la que probablemente no hemos terminado de salir pero que nos ha afectado en cualquier caso de una manera

administraciones públicas tuvieron que hacer un importante esfuerzo de racionalización en el gasto

los servicios públicos es verdad también que ese esfuerzo de racionalización venía dictado por

pero había una necesidad y un objetivo prioritario que era el mantenimiento de los servicios públicos esenciales pero esa racionalización evidentemente afectó a numerosos sectores

y como usted bien sabe también en concreto a la oferta pública que

hoy podemos compartir en términos generales que la economía mejora

más positivos y que sin perder ese objetivo de racionalizar la administración pública que debe ser un objetivo permanente en nuestra acción pública pues los tiempos son diferentes y permiten variar esas políticas

el ministerio de hacienda llegó a un acuerdo con los más importantes sindicatos de la función pública comisiones obreras

para que fruto de este acuerdo a lo largo de los próximos años en torno a doscientos cincuenta mil

los rangos administrativos puedan ser empleos estabilizados de esta forma también y fruto de este acuerdo el gobierno habilita

y a las diputaciones a que hagan esta oferta pública de empleo

pero permítame que contextualice la pregunta como en marzo no había presupuestos

el nuevo gobierno aprobó un real decreto real decreto seis barra dos mil diecisiete

las barreras que suponían al empleo público las tasas de reposición etcétera etcétera y permite una plena cobertura de las vacantes generadas pero este real decreto

dice una cosa muy concreta y cito literalmente cada administración deberá evaluar y cuantificar sus plazas vacantes negociar con los sindicatos

de plazas por el órgano de gobierno competente la pregunta por lo tanto señor erkoreka es muy

qué están haciendo ustedes para cumplir con este objetivo muchas gracias

como uno de los problemas del empleo público no solamente en euskadi en el conjunto de las

en diciembre del año dos mil quince ya recogía ese como uno de sus objetivos prioritarios el de la reducción de la temporalidad la consolidación del empleo público

y que embarrancó aquí en el parlamento y a ese designio responde uno de los compromisos del acuerdo marco de creación económica y empleo que el gobierno aprobó dos mil diecisiete dos mil veinte que el gobierno aprobó recientemente el décimo punto habla precisamente de la consolidación de empleo público

a esta cuestión incluso cuantificando a qué cantidad podía ascender

el problema que han venido teniendo efectivamente los empeños de consolidar el empleo de estabilizar el empleo público han sido las sucesivas tasas de reposición que entre los años dos mil doce y dos mil quince

con carácter general y del diez por ciento en los sectores prioritarios lo cual

parece que este planteamiento empieza a revertir

de finales de marzo de este mismo año abre la posibilidad para que se recupere parte no en la totalidad de la temporalidad

periodo a través de los mecanismos que se contemplan allí mismo

empacho alguno en reconocer que el acuerdo tiene partes es insuficiente por una parte pero es aprovechable por otra es insuficiente porque sigue

pero es aprovechable porque contiene mecanismos que no han estado presentes en la normativa básica

todavía le falta la formalización jurídica usted ha hablado del real decreto ley que solamente hace referencia a parte de esos colectivos hay otros colectivos del acuerdo que no están en el real decreto ley y que están incorporados a la ley de presupuestos del estado por lo tanto primero hay que esperar a que se apruebe la ley de presupuestos del estado y yo espero que no tenga dificultades

no tenga ninguna duda de que los resquicios aprovechables del acuerdo suscrito por el ministerio de hacienda con

que permitan adoptar medidas avanzar en la estabilización del personal de las administraciones públicas todos en todos los sectores

algunos los que ya se pueden poner en marcha lo harán de modo inmediato sin más demora en seguridad por ejemplo porque el real decreto ley que usted ha citado les habilita directamente en otros ámbitos hay que esperar a que se apruebe la ley

si no estoy equivocado el que contempla prácticamente en una manera literal lo que contempla también

alusión antes artículo diecinueve que hasta que yo sé no ha sido enmendado artículo diecinueve que parece que se consolida y que si todo va como debe de ir será aprobado en el contexto de la ley de presupuestos generales del estado con lo cual ya tenemos el marco es verdad que

espacios de la administración pero sí en los esenciales sanidad educación policía justicia es decir aspectos por cierto que también son especialmente de su competencia

pero si puede usted aportar algo en su réplica

para qué nos vamos a engañar eskerrik asko sémper jauna

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor sémper evidentemente una ope ha de ser negociada por exigencia legal con los sindicatos

tratada debatida y a ser posible acordada con los sindicatos lo que sí le puedo decir es que es voluntad del gobierno

para avanzar en la consolidación del empleo público y en la estabilización de las plantillas que es un objetivo prioritario desde la pasada legislatura eskerrik asko

legebiltzarkideok bueno lo primero que entiendo que tengo que decir es que esta interpelación surge antes de la comparecencia de la señora artolazabal en comisión y por la publicación en la página web de irekia de las medidas para

como me he quedado con algunas dudas concretas y como ya todas saben en este parlamento que soy una preguntona oficial hemos creído que no

esta información con la señora consejera y es que cuando

y que contemplaba siete medidas establecidas en la justificación

que desglosaban una parte de las diez medidas que posteriormente la consejera nos presentó

así que tal y como planteábamos en la interpelación nos gustaría que la señora consejera desarrollase y ampliase en qué forma van a mejorar estas diez medidas

en lo que tiene que ver con la afección a las personas perceptoras en primer lugar porque entendemos que hay medidas en las que la mejora se ve claramente

poco a poco el contenido de las mismas la primera de las medidas relacionada con la reducción de los pagos indebidos y en teoría como medida genérica nos parece un acierto creemos que ya era hora de que se pusiesen medios para frenar la cantidad de pagos pero releyendo las explicaciones dadas por la consejera en la comparecencia no entendemos bien qué quiere decir cuando se limita a detallar la propuesta y parece que esté orientada a que los pagos indebidos se acumulen con más agilidad no a buscar mejores formas de devolución

había alguna cosa respecto a las unidades de convivencia y la residencia efectiva no terminamos de ver el vínculo de estos dos aspectos y nos gustaría que concretase

de la policía local van a impactar en la mejora de esa gestión para las personas sobre la identificación de las y los usuarios de lanbide y teniendo en cuenta

está queriendo decir que el uso de la biometría para el control de las personas no es siendo aislada la aplicación de esta en lanbide y no en otros servicios de la administración

que debe implementarse con una evaluación previa del impacto y sobre todo se va a implantar en un organismo autónomo que tiene muchísimo movimiento y que cualquier fallo en la identificación o en la documentación provoca dramas humanos pero además es que consideramos que es una medida que redunda en la identificación no en hacer la gestión más accesible y nos entran dudas concretas que formulo aún a sabiendas que no tiene obligación de respondérmelas por no estar contenidas en la interpelación va a implicar que ya no se pida la documentación identificativa

estando trabajando no pueden acudir a entregar personalmente esa documentación y hay en la ley habilitados mecanismos para que lo hagan personas en su lugar la implantación de la huella digital

pero se pueden y de deben dar pasos previos para asegurarnos de su buen funcionamiento

que no podemos olvidar en su totalidad son un colectivo que merece especial protección por parte de la administración espero que con esto que digo usted no disienta porque son palabras formuladas por la señora arregi

parlamento sobre el rechazo a las ofertas de empleo y formación

la consejera artolazabal en su comparecencia y cito textual alegando situaciones diversas de tipo personal o familiar y nos preguntamos dónde quedan las medidas para facilitar la conciliación especialmente importante para tantas mujeres que están solas con menores a cargo proponen medidas para identificar cuál es el empleo adecuado en cada persona está bien

es eso incentivar la activación laboral como se planteaba en la nota de prensa publicada por irekia nos parece grave que en orden a esto se equiparen despidos con bajas voluntarias o se tenga que pedir entre comillas permiso a lanbide para mejorar un empleo

tendrán las personas en torno a elementos tan importantes como mejorar o modificar su empleo en relación a la medida que tiene que ver con el rediseño

ya le comenté en la comparecencia que me parecían buenas medidas si bien me siguen quedando

sobre la unidad anti fraude y a la espera de su respuesta quiero hacer dos afirmaciones la primera

el sistema de garantía de ingresos y ustedes mismas en el pasado coinciden en que no existe un nivel significativo de fraude porque desde su inicio este ha estado

y la segunda es que el hecho de que una persona cometa un delito un fraude una extorsión

no hace culpable al resto y vuelvo a traer aquí palabras que no son mías sino de la señora sarasua del partido socialista podría indicarme concretamente las personas beneficiarias de la rgi

la creación de esta unidad antifraude en relación a aquellas medidas que tienen que ver con la comunicación del sistema de prestaciones sociales podría detallar en qué van a consistir y qué beneficios concretos se espera de ellas para las personas vaya por delante que no es la primera vez que digo en esta tribuna que me parece más que oportuno e indispensable informar a la ciudadanía y por lo tanto no estoy manifestando

por último en la comparecencia nos hablaba de indicadores de calidad en el procedimiento de tramitación y para este año dos mil diecisiete está previsto terminar con la definición del modelo de gestión de calidad nos gustaría que nos ampliase información sobre el enfoque de esta gestión de calidad si incorpora o no perspectiva de género perspectiva de derechos porque entendemos que no es lo mismo implementar un modelo de gestión de calidad en un supermercado en una metalurgia que en una oficina de lanbide

en la atención a las personas estoy segura de que usted me lo va a poder aclarar mila esker eskerrik asko guanche andrea artolazabal andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi señora guanche desde nuestra responsabilidad como gobierno

una serie de medidas dirigidas a la mejora en la gestión control e información del servicio que presta lanbide a la sociedad a las personas perceptoras

eskatuta hoy vuelvo una vez más a detallar el desarrollo de las medidas que estamos poniendo en marcha

desde el departamento de empleo y de políticas sociales trabajamos para mejorar la gestión y la eficacia de las medidas que desarrollan en el ámbito de lanbide y en los pocos meses

lo estamos evidenciando la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda han evitado que más de ciento treinta mil personas padezcan la pobreza en euskadi

y debe estar en continua revisión para mejorar su eficiencia consiguiendo así un sistema justo

las medidas que hemos puesto en marcha están dirigidas a agilizar las tramitaciones de las personas usuarias a optimizar el trabajo en las oficinas a ofrecer un modelo único de atención a la ciudadanía a promover y mejorar una mayor coordinación con las administraciones y a mejorar también el control de dichas ayudas

es ante todo mejorar la atención a todas las personas a todas las personas usuarias de los servicios de lanbide no solamente los que reciben la prestación de la rgi ofrecer también

una búsqueda activa de empleos y también mejorar el proceso de gestión de la renta de garantía de ingresos por supuesto esa mejora se traduce en facilitar que las personas destinatarias de la prestación dispongan de una tramitación más sencilla que tengan respuestas más rápidas

a la hora de realizar los trámites pertinentes y al mismo tiempo abrir a toda la ciudadanía este sistema para su mayor conocimiento y para su mayor valoración por parte de los mismos me pregunta exactamente usted en qué aspecto de forma concreta se va a mejorar esta gestión

en las anteriores comparecencias de explicarme adecuadamente pero bueno las mejoras que nosotros hemos puesto ya en marcha algunas

en primer lugar la reducción de los pagos indebidos gracias a una mayor coordinación con la tesorería general del estado que posibilitará el cruce masivo y en tiempo real de la información con el objetivo de que las personas no se vean obligadas a realizar devoluciones económicas que le supongan un perjuicio aquí lo que pretendemos es reducir

deuda adquirida con la administración y la tengan que devolver lo que tenemos que evitar es que se produzcan esos pagos para evitarles ese perjuicio en cuanto a las unidades de convivencia y residencia efectiva

y de esas unidades de convivencia y hemos mantenido ya numerosas reuniones con los ayuntamientos de euskadi y

qué es una unidad de convivencia y existe algunas situaciones que tenemos que mejorar y que tenemos que arreglar estamos modernizando también el servicio de coordinación

es una organización y es una empresa que tiene experiencia en la acreditación de lo qué es la nuevas tecnologías y que nos están ayudando a la hora de implementar

las gestiones no solamente del control de agilizar las cuestiones y de facilitar los trámites a las personas que se relacionan con lanbide y a los propios trabajadores de lanbide

se trata de un sistema adecuado y seguro que cumple el principio de transparencia modernización y calidad en el trato a la ciudadanía y además que ya está implementado en otras administraciones

mejoramos también la gestión definiendo con detalle lo que es un empleo adecuado para facilitar la labor de orientación tanto en el acceso

con ello vamos a mejorar la empleabilidad de cada persona se producen dificultades a la hora de ofrecer usted también lo conoce perfectamente y rechazos porque además podemos no haber acertado a la hora de poder ofrecer a esa persona un trabajo

lanbide ha de ofrecer también un servicio eficaz homogéneo y equitativo y era necesario establecer un criterio para todas las oficinas y por ello estamos revisando el procedimiento diferenciando entre las etapas de atención y resolución y luego lo que son las etapas de control y verificación para ello realizamos un análisis de las cargas de trabajo de las oficinas para saber

dentro de lo qué es la organización de lanbide ver cada nivel a qué se tiene que dedicar y cuáles tienen que ser sus funciones

de quienes trabajan allí de su plantilla y que son parte fundamental de este proceso para ello trabajamos ya en el reparto de las cargas de trabajo en mejorar su formación

en coberturas de vacantes y también en el establecimiento de posibles de un protocolo ante posibles agresiones porque también usted es consciente de que se dan como en otros

también trabajamos para ofrecer una respuesta más rápida y adecuada a los recursos que generaban atascos porque existían un problema

de responder y estamos definiendo de una mejor forma el procedimiento y tramitación de la renta de garantía de ingresos determinando qué documentación necesaria

y aunque como usted bien sabe y así también nosotros le hemos dicho el porcentaje de fraude es muy pequeña el uno por ciento rondará más o menos debemos ser conscientes de su existencia

a lo qué es la renta de garantía de ingresos hemos de proteger y defender este sistema de protección construido con el esfuerzo de todos y todas las vascas de la sociedad en su conjunto y para ello vamos a crear un grupo antifraude ya estaba

a crearse que agrupe diferentes servicios porque el problema del fraude o el problema de la situaciones inadecuadas o incorrectas tiene diferentes vertientes

la parte jurídica como tiene problemas que tienen que ver con otra índole y en el que las oficinas locales de lanbide también están participando así mismo y para mejorar del conocimiento por parte de la sociedad de los contenidos de la nueva ley vamos a divulgar los conceptos y objetivos y destinatarios de la ley ya se publicaron en la web de lanbide

para una eficaz consulta no solamente de los perceptores sino también de los profesionales a los que vamos a aplicar un sistema de lectura fácil y también vamos a incorporar en esa web videos tutoriales para que las personas usuarias conozcan mejor la tramitación de la prestación

para ello realizaremos comunicaciones periódicas esto ya se lo he contado en numerosas ocasiones desde el gobierno estamos poniendo un especial empeño en mejorar los indicadores de calidad del servicio y en trasladar esos avances a la opinión pública ese servicio de calidad

una calidad que garantice que la tramitación se hace de forma ordenada como cualquier otra organización

foral o cualquier otra empresa que lleve a cabo adelante un servicio eficiente y eficaz pero con estándares de calidad

hemos iniciado un gran avance y mejora tanto en lanbide como en la gestión de la rgi y con eso no traslado

somos conscientes de la necesidad de una mejora y para ello estamos trabajando desde el inicio de la legislatura y concluyo la actualización y mejora permanente de la gestión de lanbide

pero es un sistema que debe estar en permanente revisión para optimizarlo consiguiendo que sea más justo solidario y que responda a las necesidades de la ciudadanía vasca

bueno eskerrik asko lehenik eta behin es verdad que usted ya había respondido y yo se lo agradezco es verdad que esto ya se había tratado y por eso me he limitado a tratar por qué volvía a traer la interpelación

me voy como vine porque no termino de resolver las dudas usted traslada que el objetivo es claro agilizar la gestión en algunas medidas tal y como le he relatado yo lo veo claro

me entran dudas yo le repito por si acaso igual me puede resolver alguna

en la comparecencia que se aplicaría un aplicativo

temporal cito textual para detectar la variación de la situación del perceptor y comunicar individualmente yo no entiendo muy bien

de las unidades de convivencia eso lo entiendo lo que no entiendo es qué relación hay tan estrecha entre las unidades de convivencia y la residencia efectiva creo que son dos cuestiones diferentes y hay que tratarlas como tal

insisto en mi pregunta qué margen de decisión van a tener las personas y soy consciente de lo pequeño que es el fraude y he dicho en múltiples ocasiones en esta tribuna y en las comisiones

que no haya que luchar contra el fraude en la renta de garantía de ingresos por pequeño que sea pero en la comparecencia del diez de abril usted dijo que este paquete de medidas antifraude

comportamientos fraudulentos presentes o posibles

y me preocupa ese posibles porque no sé si estamos hablando de prevención o estamos hablando de criminalización de la pobreza cosa que es algo

los delitos corresponden a las personas con nombres y apellidos no a colectivos ni a organizaciones ni siquiera a personas

que sean del mismo color y esto ya viene de otro sitio y ya no sigo los delitos son de las personas y por eso

entra en contradicciones con lo que me está diciendo aquí cuando se implanta una medida de persecución o una unidad de persecución del fraude planteando los posibles estamos ya dando por hecho

usted dijo también el día diez que era un avance utilizando por si no lo sabe unos argumentos bastante parecidos a los del señor maroto en el año dos mil quince

concreto es evidente que los sistemas de las nuevas tecnologías deberán incorporarse para mejorar los sistemas de la administración pública

a cualquiera que sea perceptor de la rgi en lanbide yo creo que no tiene por qué ser una mala opción en sí

en lanbide para las perceptoras y para las que no son perceptoras

el otro día decía el señor alfonso alonso que

yo sinceramente espero que con su réplica hoy me pueda aclarar las dudas y sobre todo que con sus medidas de ahora en adelante nos demuestre

con ataques al sistema de garantía de ingresos romper la cohesión social en torno a él sigo diciendo que me voy como al principio

pero sí que creo que las personas perceptoras no se ven reflejadas en ellas y que es un deber mencionarlo eskerrik asko

yo no tenía intención de comentarle una serie de cuestiones pero claro si usted me lo

del que se ha dotado durante muchos años con la ayuda de todos los grupos políticos que han participado en esta cámara independientemente de su ideología y del que nos sentimos muy orgullosos

ustedes de que estamos poniendo en riesgo cuando eso no es verdad pues me molesta me molesta también que

intente equiparar las medidas que este gobierno ha puesto en marcha y las que va a poner con las

cuestiones que el señor maroto defendía en la legislatura pasada que en nada se le parecen ni en nada tienen que ver nosotros

es proteger el sistema de renta de garantía de ingresos y para eso vamos a poner en marcha todas las medidas que tengamos a nuestro alcance

circunscriben a personas que generan situaciones fraudulentas

problemas muy importantes y que tenemos que echarles una mano en esa situaciones tan complicadas

y asociar la pobreza con criminalización lo dice usted yo para nada lo digo ni lo comparto además lo rechazo taxativamente

cuando están hablando de colores de personas de razas y demás yo en mi discurso hoy ni en los anteriores y usted lo conoce perfectamente señora guanche

jamás he dicho nada parecido y desde luego

ni yo ni mi grupo en cuanto a los pagos indebidos pues qué decirle lo que pretendemos es que no existan

tenemos que seguir haciendo cosas nosotros en lanbide tenemos un programa informático que lo que va a pretender es informar

infórmame para que yo no genere una nómina inadecuada

o que vayas a tener tú un problema en el futuro ese es el objetivo nada más además le dije

utilizando las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación con la administración

cuestión yo sí que quería también poner en valor las medidas los efectos y las consecuencias de esas medidas

la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión va a permitir una mejora tanto en la atención como en la gestión de la misma y tenemos que implementar y normalizar

avances que nos está permitiendo la tecnología mientras se da esa reflexión y llega un debate más sosegado debemos ir avanzando y distingamos por tanto lo que tiene que ver la posible reforma de lo que es la ley de lo que son las medidas concretas

trabajamos para reducir la tasa de paro y para que sean más las personas que se incorporan al mundo laboral y las cifras que conocimos ayer lo confirman y también las cifras que conocemos confirman que los perceptores de renta de garantía de ingresos están disminuyendo y están disminuyendo y eso es algo que nos tenemos que alegrar porque esta gente está pasando al mercado ordinario

constante en el número de titulares de unidades convivenciales

en cuanto a los cuatro primeros meses del año dos mil diecisiete se cuentan seiscientos cincuenta y uno expedientes menos que al finalizar el año dos mil dieciséis y el saldo interanual se cuentan que hay dos mil trescientos sesenta

una mejor gestión de esta prestación social unida a una mejoría en el mercado laboral son las principales razones que explican esta disminución en el número de personas perceptoras de esta renta básica el descenso está siendo más acusado entre los hombres y también

personas que tienen una edad inferior a los treinta y cuatro años la inserción laboral es más fácil entre los jóvenes hecho que favorece que en buena

la recuperación económica genera más oportunidades de empleo

sí gracias señora presidenta señor consejero en el ejercicio dos mil dieciséis la partida de gastos de personal de ura agencia vasca del agua tenía

cuatro altos cargos veinte funcionarios ciento treinta y cuatro plazas laborales

es decir novecientos veintiséis mil seiscientos noventa y siete euros más que en dos mil dieciséis

cuatro altos cargos quince funcionarios ciento treinta y nueve plazas laborales se reduce en cinco funcionarios y aumentan cinco laborales

además en el ejercicio dos mil diecisiete figura en gastos de personal una indemnización de trescientos veinticinco mil euros que nos gustaría saber a qué corresponde y aún queda

a qué corresponde ese aumento que usted plantea en esa partida presupuestaria

gracias presidenta señora lópez de ocariz

tanto en el ejercicio dos mil dieciséis como también en el dos mil quince se ha mantenido constante al cierre

la plantilla por categorías era la siguiente cuatro puestos de alta dirección ciento dieciocho personas de personal técnico y mandos intermedios

personas como usted también dice los gastos de personal para dos mil dieciséis se cifraron inicialmente en los presupuestos de ura

pero durante el ejercicio dos mil dieciséis se realizó una modificación de créditos que elevó esta cantidad hasta los ocho millónes

se produjo como consecuencia de la aplicación de los resultados de la relación de los puestos de trabajo aprobado

y es que la vigente relación de puestos de trabajo de ura fue aprobada en dos mil quince por su consejo de publicación y publicada en el boletín oficial de país vasco el treinta de octubre de dos mil quince

la práctica totalidad de la plantilla de ura pasó a la condición de contratados laborales y se realizaron nuevas valoraciones lo que conllevó

y administrativo seguramente como consecuencia de las fechas en que se produjo este proceso

no fueron recogidos en el presupuesto inicial de ura

realizar esa modificación de créditos a la que le he hecho referencia

para el presente ejercicio como usted también comentaba en su pregunta el gasto de personal presupuestado es de nueve millónes doscientos cincuenta y siete mil trescientos trece euros

el incremento sobre el gasto del año dos mil dieciséis se debe principalmente también hacía referencia a una provisión de trescientos veinticinco mil euros como consecuencia

de la agencia se contempla además el incremento salarial del uno por ciento previsto para los empleados y la cobertura

en la relación de puesto de trabajo aprobada eskerrik asko arriola jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza

señor consejero usted recordará que yo cuando presentó los presupuestos le hice pregunta sobre esta cuestión y no me contestó ni me contestó en el momento ni me contestó luego por escrito que hubiese sido algo

me dice ahora que es un ajuste del año dos mil dieciséis y que eso supone

aún así y me dice que va a provisionar tres plazas pero no creo que las tres plazas supongan trescientos mil euros

de verdad creo que usted tiene previsto algo más y quiero que me lo cuente lo iremos viendo probablemente pero

es una impresión mía personal probablemente no acierte pero es lo que me transmite

y por eso dudo tanto de usted porque sencillamente le cuesta mucho ajustarse a la realidad y contar los hechos como son yo voy a hacer seguimiento de lo que usted vaya haciendo y me gustaría que

nos lo cuente realmente como es yo no le voy a decir si hay más necesidad o no

lleva la dirección de ura y si ura necesita más personal

lo aceptaremos pero ese esconder lo que en realidad tiene previsto hacer piense que es que me da mucho que pensar

señora lopez de ocariz no sé por qué me dice lo que me dice

en mi intervención y le he comentado hay un diferencial

que cubre la consecuencia de la relación de puestos de trabajo que suponen las valoraciones

final del dos mil dieciséis y el presupuesto inicial dos mil diecisiete hay un diferencial

de los cuales trescientos veinticinco mil se deben a una provisión de fondos

el uno por ciento de incremento salarial el uno por ciento de incremento salarial a los trabajadores y la cobertura de tres plazas vacantes no le dan las cuentas

no le dan las cuentas a usted a mí sí me dan las cuentas y más no hay

teniendo la referencia de los datos que le he dado a usted

duda de que no tengo nada más que ocultar en este asunto y que al médico

y también aquí eskerrik asko

de fatiga crónica son enfermedades complicadas graves enfermedades incluidas dentro de sensibilización central por tanto son enfermedades que afectan al sistema nervioso el diagnóstico es clínico pero no hay pruebas

claras para realizar dicho diagnóstico actualmente se puede decir que no existe ningún tratamiento curativo específico pero sí

la aparición de dichas enfermedades hay problemas para realizar un diagnóstico certero desde el primer momento y en la mayor parte de los casos se necesitan además unos siete años para ser diagnosticados argi dago bi gaixotasun hauek konplexuak direla

biztanlerian está claro por lo tanto que estamos ante enfermedades complejas complicadas pero a la vez también estas enfermedades tienen una mayor incidencia entre la población y también entre la población vasca se puede decir que afectan al cuatro por ciento de la población siendo el noventa

gaixotasun kronikoak dira eta bizitza pertsonalean eta familiaren bizitzan eragin handia dute por lo tanto como he señalado son enfermedades crónicas y tienen un impacto

la fibromialgia se caracteriza por un dolor generalizado presenta entre otros síntomas dolor osteomuscular generalizado crónico fatiga problemas

entumecimiento de ciertas partes del cuerpo y trastornos del sueño entre otros el síndrome de fatiga crónica lo que predomina es la fatiga el cansancio el agotamiento fuerte y prolongado en el tiempo

con el descanso presenta además un amplio espectro sintomático que abarca cefaleas ansiedad y síntomas depresivos

y a ello también contribuye de alguna forma la falta de formación específica que tienen los médicos tanto en atención primaria como en atención especializada los pacientes se someten a un peregrinaje por distintos especialistas en busca del ansiado diagnóstico

y de numerosas pruebas hemos tenido en esta cámara como señalaba diversos debates también se han alcanzado acuerdos hemos tenido comparecencias

hemos considerado conveniente conocer por parte del gobierno vasco cuáles son los propósitos en relación a estas dos enfermedades cómo se van a abordar a lo largo de estas legislaturas cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico el tratamiento la formación de los especialistas tanto de atención primaria

especializada todo lo que tiene que ver con la detección y tratamiento de estas enfermedades y con la promoción de acciones que mejoren la calidad de vida de los enfermos

el programa de gobierno del gobierno vasco y también las líneas de la comparecencia sustanciada en esta cámara

del departamento por parte del consejero no vimos una referencia específica a estas dos enfermedades en relación con actuaciones concretas para poner en marcha a lo largo de esta legislatura creemos que tiene que haber una continuidad en

emprendido por parte del gobierno vasco por impulso también de esta cámara en relación a la actualización y elaboración de protocolos para la atención de estas enfermedades en relación a mejorar la coordinación entre los médicos de atención primaria y especializada con el objetivo de conseguir ese diagnóstico temprano un mejor seguimiento de la evolución clínica y del tratamiento de los pacientes diagnosticados y también para evitar la sobremedicación en muchos casos

una mayor colaboración y coordinación con otras comunidades para desarrollar líneas de investigación en las enfermedades de sensibilización central y desde luego establecer cauces de comunicación y colaboración permanente con las asociaciones de enfermos afectados por ello por todo ello

interpelación al gobierno sobre las intenciones en relación a las actuaciones

ikastaroekin eta azkenik koordinazioa eta elkarlana hobetzearen bidetik no es que el gobierno vasco tenga intención de promover

llevamos al menos dos legislaturas trabajando en este ámbito en los últimos años se ha realizado una labor importante en el ámbito de la formación

así como también en relación y en la relación y colaboración con las asociaciones de pacientes y específicamente con los pacientes afectados por estas enfermedades

veo que presenta como justificación de la interpelación exactamente el mismo texto de otra proposición no de ley

proposición no de ley que no fue aprobada sino que se aprobó una enmienda transaccional con un texto alternativo algo más ambicioso que el planteado inicialmente

volvió a presentar de nuevo el mismo texto de la justificación esta vez en dos mil trece

al formular otra proposición no de ley idéntica con parecido resultado tampoco fue aprobado

esta vez firmada por el grupo nacionalistas vascos y por el grupo eh bildu de cuyo cumplimiento informamos debidamente a esta cámara en la anterior legislatura

en todo caso no tengo ningún inconveniente en informar de las actuaciones que se llevan a cabo en relación a la fibromialgia y al síndrome de fatiga crónica

creo que han sido muchas y con buenos resultados pero es importante también reconocer y dar un sentido de normalidad a estas

y no pensar que se les trata peor que a los demás porque no es cierto en mi comparecencia para presentar las líneas estratégicas de la legislatura o los presupuestos para este año no nombré la fibromialgia o síndrome de fatiga crónica como tampoco nombré al diabetes o la hipertensión o como tampoco nombré la insuficiencia cardiaca o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

que normalizadamente afectan a sociedades avanzadas como la nuestra quisiera aclarar que la fibromialgia es una enfermedad reconocida por la organización mundial de la salud

y por lo tanto figura en el currículum de todas las facultades de medicina desde entonces y también desde entonces

de psiquiatría de psicología también reciben durante su periodo postgrado formación al respecto está tipificada en el manual de clasificación internacional de enfermedades

que es la que actualmente utilizamos sin embargo como usted ha dicho

lo cual como en otras entidades de estas características hace más difícil su comprensión y también su visualización de hecho

en la propia comunidad científica han existido posturas y teorías diversas

en euskadi sino a nivel mundial en cualquier caso la realidad es que afecta aproximadamente en euskadi nosotros pensamos que entre el dos y el tres por ciento de la población las características de la enfermedad que usted ha relatado y el hecho de que su origen sea desconocido

de forma que las personas afectadas reciban una atención adecuada a sus necesidades basada sobre todo en la mejor evidencia científica disponible

en los últimos años a nivel mundial se han realizado diversos ensayos clínicos que ha enriquecido la literatura científica y han producido un avance considerable en el conocimiento de la enfermedad hau guztia

bideak mantentzea de este modo en la línea de lo establecido en el acuerdo parlamentario hemos trabajado fundamentalmente en la formación a profesionales

de pacientes en la investigación y en la mejora de la coordinación de los recursos para tratar a los pacientes afectados por este grupo de enfermedades

formado por expertos que diseñaron y desarrollaron sesiones clínicas sobre fibromialgia y otros síndromes de sensibilización central

por los profesionales de atención primaria con el objetivo de sensibilizar

dar a conocer los últimos avances de consenso internacional y actualizar los conocimientos de estas patologías las sesiones se han impartido en los centros de salud de araba bizkaia y gipuzkoa y han asistido a día de hoy

se han organizado talleres específicos de formación para otro tipo de profesionales también relacionados como fisioterapeutas psicólogos inspectores médicos etcétera en total han sido mil ochocientos veinte

en relación a esta enfermedad que como digo desde su descripción y aceptación por parte de la oms figura en los currículum de pregrado

por otra parte también hemos celebrado cursos con grupos de pacientes en total se han organizado diecinueve cursos en los que han participado más de trescientos pacientes

y jornadas científicas tanto de medicina como de enfermería y se han realizado actividades en centros cívicos y con asociaciones

como puede ver han sido muchas las actuaciones realizadas en los últimos años en el ámbito de la formación y sensibilización tanto a profesionales como a pacientes de hecho consideramos que la formación

de su problema de salud y en consecuencia en beneficio del mismo

mejorar la coordinación entre primaria y especializada cabe recordar que este es uno de nuestro principales ejes de actuación en el contexto de la atención sanitaria

y al resto porque si lo que intentamos es no segregar a ningún tipo de paciente por aquella enfermedad que le afecte estamos convencidos que las acciones generales

de la intervención comunitaria han redundado en beneficio de los pacientes afectados por fibromialgia

insistir en que han existido y van a continuar existiendo líneas de comunicación y colaboración abiertas con las diferentes asociaciones de afectados

de las intervenciones así como también en las jornadas que periódicamente se organizan en definitiva si bien estamos ante una enfermedad compleja

es aún desconocida cuyos criterios diagnósticos son cambiantes ya han suscitado multitud de debates estamos convencidos

atención y recursos y estamos también convencidos de que las actuaciones realizadas han contribuido de manera importante

del diagnóstico y tratamiento en definitiva a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y vamos a continuar insistiendo con ellos

de pacientes de cualquier otro tipo de enfermedades eskerrik asko

por todas las explicaciones en relación a las actuaciones

a si esas actuaciones van a tener continuidad creo que de sus palabras se puede desprender que sí en cualquier caso desde el grupo popular nos alegremos de que este tema esté en la agenda del departamento y del gobierno

interpelación fue motivada inicialmente porque no hubo una referencia expresa en la comparecencia

pero a una de las cuestiones que como usted bien ha dicho se puso en la agenda

gobernando el partido socialista siendo consejero el señor bengoa a raíz de

del partido popular una proposición no de ley que fue además acordada por una enmienda de transacción de todos los grupos con representación en esta cámara que básicamente respetaba el texto original presentado por el partido popular

legislatura la pasada legislatura el dieciséis de mayo del dos mil trece no se llegó a un acuerdo porque nosotros entendíamos que

era lo ambicioso que requería el momento en relación al abordaje de estas dos enfermedades pero en cualquier caso es positivo que

se haya abordado todas las cuestiones que tienen que ver con esta enfermedad compleja como señalaba usted con características propias que son enfermedades crónicas

que hace también que los enfermos y sus familiares

de desesperación al verse sometidos o tener que estar en médico en médico ese peregrinaje que les lleva

múltiples pruebas diagnósticas múltiples visitas a distintos especialistas también tiene una característica propia porque la mayoría de las afectadas son mujeres el noventa por ciento de las afectadas son mujeres también trajimos otra

a raíz de esa iniciativa se elaboró también un plan

a las mujeres en cualquier caso señor consejero seguiremos haciendo un seguimiento de esta cuestión de todo lo que tiene que ver con la formación de médicos con la coordinación del ámbito de la atención primaria y especializada también con los cursos que se realizan a los pacientes con la investigación

este tema a raíz de varias iniciativas del partido popular se puso en la agenda de este gobierno también en línea con las demandas de las

asociaciones y también tener testimonios de primera mano muy clarificadores de lo que sufren estas personas con estas enfermedades

que haya acciones específicas dirigidas no solo a los enfermos

para paliar los efectos que tienen en los pacientes y sobre todo con el objeto de mejorar la calidad de vida puesto que son enfermedades crónicas

lehen aipatu ditudan ekintzak coincido con usted en que vamos a continuar prestando atención pero coincido también créame que es muy importante no generar no segregar a pacientes por el tipo de enfermedad y lo que ocurre desgraciadamente con los pacientes afectados por los síndromes relacionados con la

no es diferente en euskadi que en el resto de sistemas sanitarios las enfermedades que tienen una etiología desconocida y que no tienen una prueba diagnóstica

a través de una prueba radiológica a través de una biopsia siempre ocurre que el diagnóstico es más tardío

se consiguen mejores resultados a veces se cansa la gente prácticamente

los resultados que tenemos con los profesionales son francamente buenos y nadie diría que porque

donde el ochenta y cinco por ciento de las personas que trabajan son mujeres les atendemos peor y eso permítame que me parecería aceptable la formación es uno de los aspectos más demandados por las

por ello como ya he dicho osakidetza recurrió a un grupo de expertos en la materia

en las sesiones formativas a profesionales que como decía es una de nuestras principales profesionales se ha difundido

y sí me gustaría poder recordar que la información que hemos difundido han sido los últimos criterios diagnósticos para la fibromialgia del american college of rheumatology

editado por el ministerio de sanidad políticas sociales e igualdad los criterios de consenso internacional

el documento de consenso de sensibilidad química múltiple también del ministerio de sanidad políticas sociales e igualdad que también ha prestado interés a estas enfermedades

así como diferente información también a los pacientes sobre los servicios y la ubicación de las asociaciones de afectados por estos síndromes tanto en álava

como en gipuzkoa somos conscientes de que los cursos

han tenido una gran aceptación y continuamos recibiendo solicitudes para asistir a los cursos además lo vuelvo a repetir mantenemos y vamos a mantener abiertas las vías de comunicación y colaboración con las asociaciones de personas afectadas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos pacientes la semana que viene será el día mundial

y el síndrome de fatiga crónica pero insisto para nosotros

tienen una derivada un componente de necesidad de tratamiento y de apoyo también

y darle un concepto de normalidad dentro del sistema sanitario es importante para nosotros también destacar que las sesiones formativas a pacientes se ha llevado a cabo un ensayo clínico

concretamente trescientos nueve pacientes que estamos a la espera de poder analizar los resultados especialmente vamos a valorar cuál ha sido

y que esperamos que estén disponibles a lo largo del año dos mil dieciocho laburbilduz

y el objeto es el que todos conocemos promover la creación cultural contemporánea en diferentes ámbitos y en todas sus fases investigación producción exhibición

bien según hemos conocido a través de informaciones periodísticas

requiere más intercambio de información más comunicación tanto interna como externa más seguridad vigilancia de las instalaciones más flexibilidad por parte de la dirección más coherencia entre las distintas

identificadas como conclusiones de recomendaciones de ese informe elaborado que analiza las reclamaciones del llamado ecosistema

y esos cambios estratégicos en su funcionamiento

que se nos envíe a los grupos parlamentarios a la comisión de cultura pero en cualquier caso usted señor consejero

de tabakalera y sí que nos gustaría que nos diese información y que hiciese una valoración en relación con esa serie de recomendaciones conclusiones alguna de ellas

identifican una necesidad de mejorar muy mucho

el ecosistema pero sobre todo el propio funcionamiento de tabakalera y que nos diga qué

es un amplio edificio de una gran t un gran contendor que acoge

es también una instalación con expectativas de convertirse en una nueva avenida urbana

y la habitabilidad en la ciudad a esta nueva comunidad de vecinos creativos que ha surgido en el seno de la antigua fábrica a sus gestores les gusta llamarle ecosistema en él conviven instituciones como el festival de cine de san sebastián zinemaldia el instituto etxepare la filmoteca vasca

también operan desde allí diferentes iniciativas privadas como

el sekadero un espacio dedicado a organizar talleres y performances nana iniciativa de servicios profesionales de arte y diseño en gestión cultural

o lantoki todas ellas tienen su propia cultura y organización y han iniciado una nueva etapa en una nueva ubicación

en un entorno nuevo y diferente para ellas por encima de todas estas citadas está el proyecto cultural propio de tabakalera impulsado por el propio centro orientado

la diputación foral de gipuzkoa y el gobierno vasco y como gran contenedor de todas estas iniciativas está el propio edificio tabakalera

por las instituciones e iniciativas que le he citado que además se ha convertido en una gran plaza pública que los ciudadanos donostiarras han hecho suya y atrae a miles de visitantes vascos y turistas que nos visitan en él hay actividades relacionadas con la creación cultural exposiciones de obras artísticas y audiovisuales procesos y espacios creativos un semillero de empresas creativas talleres bibliotecas conciertos cine clases de baile teatro

un acontecimiento que inundó de actividad los espacios de tabakalera

para abordar las exigencias que su puesta en marcha imponía en ese sentido creo que el trabajo realizado por la dirección y el equipo técnico que trabaja en tabakalera fue

y a todas las instituciones públicas y privadas que el edificio acoge su objetivo es identificar las fortalezas del proyecto las disfunciones que se puedan estar produciendo e identificar las mejoras que sea necesario adoptar en un nuevo escenario sin la presión de la capitalidad

impulsado por el propio equipo gestor que destaca algunas fortalezas que intuyen y declaran tanto los gestores del edificio las diferentes instituciones que en él habitan se ha considerado conveniente analizar la convivencia de las diferentes marcas que integran tabakalera

aspectos relacionados con la comunicación de las múltiples actividades que se desarrollan en él se trata de un proceso de reflexión y mejora que toda institución debe plantearse

para consolidar el proyecto tabakalera y mejorar la satisfacción y las expectativas de sus inquilinos usuarios y visitantes eskerrik asko eskerrik asko

en la prensa y el informe también la memoria de dos mil dieciséis y por eso llamaba la atención que un proceso que ya se ha puesto en marcha que lo haga con ese nivel todavía de cuestiones por atar

por ejemplo dentro de lo que es la memoria dos mil dieciséis se habla de cinco pasos importantes

eso tiene que ser así se había inaugurado a finales de dos mil quince pero en ese sentido el fin de la obra a lo largo del dos mil dieciséis pero luego estaba

ese informe denota más necesidad de coherencia

eso está en el informe dentro de lo que es el ecosistema se habla

mencionado los miembros del ecosistema el conjunto de proyectos que convivimos dice la memoria en tabakalera que conformar se llama ecosistema cultural el descontento al parecer dificultades para negociar con el centro o sea son cuestiones que aparecen en ese informe que hemos podido detectar

el cuarto de los puntos importantes en la memoria hablaba de los públicos del público tabakalera ha demostrado ser un lugar para todos los públicos bien en relación con el público también se han identificado en ese informe que no conocemos pero que hemos tenido referencia a través de los medios de comunicación de dificultades en diferenciar de las distintas actividades exteriores eso se ha dicho en el propio informe e incluso hay algunas cuestiones que afectan a la seguridad incluso algunas cuestiones que afectan a la logística normal y al desenvolvimiento normal que tiene que ver con el restaurante que tiene que ver con la cafetería o sea que todavía están en una fase

y hay otra de las cuestiones y es la quinta cuestión de la que habla

ecosistema proyecto cultural público y comunicación y posicionamiento

la memoria pero en cualquier caso se dice y dice el informe necesidad de comunicación más fluida con las instituciones del ecosistema tabakalera está bien claro señor consejero que
tabakalera tiene todavía un recorrido muy importante por andar eskerrik asko barrio jauna gai zerrendako

egun on guztioi la situación de la negociación colectiva en la comunidad autónoma vasca realmente grave en las últimas semanas hemos tenido oportunidad de escuchar la comparecencia que han realizado los principales agentes socioeconómicos entre ellos los principales sindicatos

y en ella en esas comparecencias han sido prolijos en sus calificativos

de la negociación colectiva a día de hoy en nuestra comunidad entre otros adjetivos han utilizado los de bloqueada paralizada agonizante muerta

etcétera etcétera pasemos de lo adjetivo a lo objetivo

estos calificativos y ahí podemos constatar que más del sesenta por ciento de la ciudadanía de este país que está asalariada a día de hoy no cuenta con un convenio en vigor que proteja sus derechos laborales y salariales incluso el consejo

hasta el setenta y cuatro por ciento el setenta y cuatro por ciento de los trabajadores y trabajadoras de este país en estos momentos tendrían sus convenios bien decaídos bien sujetos a una ultraactividad

de ciento quince convenios dieciocho están actualizados cincuenta y seis están decaídos y cuarenta y uno están sujetos a esa ultraactividad no blindada a la que hacía referencia

se van a deteriorar y efectivamente así ha sido en los últimos años lan baldintzak gero eta kaxkarragoak direla prekarietatea bete betean jo du

es con que la población asalariada se está empobreciendo si medimos

la economía va bien si medimos la economía en función de cómo le van los sueldos de cada una de las personas que componen

la economía va mal la mayoría es cada vez

hablar de mileurismo era referirse a esa gente que estaba en el borde

hoy en día con mil euros tampoco se puede vivir como no se podía vivir dignamente y con un planteamiento a futuro hace diez años pero ya no es marginal por lo menos en términos cuantitativos porque el veinticinco por ciento de los asalariados y asalariadas de este país menos de mil euros y es más el cincuenta por ciento cobra menos

esa es la realidad que se esconde detrás de algunos titulares con los que algunos hacen propaganda un día sí y otro también y hay razones para que la negociación colectiva esté paralizada

en primer lugar que la patronal cuenta con los instrumentos jurídicos para bloquear la negociación colectiva y en segundo lugar que la patronal tiene la voluntad subjetiva

esos instrumentos con los que cuenta para efectivamente establecer el bloqueo sobre la negociación colectiva y ello es posible porque los sucesivos gobiernos del partido socialista y del partido popular han puesto esos instrumentos en manos de la patronal fundamentalmente todos los sindicatos han recalcado algo que ya es sabido y es que la pérdida de ultraactividad de los convenios

fundamentales en manos de la patronal para poner patas arriba y paralizar por completo la negociación colectiva tal y como está sucediendo a la patronal le basta con sentarse en la mesa y no hacer nada

para luego poder implantar unilateralmente las condiciones laborales que determine eta hau da herri honi inposatu zaion gauza bat

hau egiten da arrazoi zehatz batekin cuando el gobierno implanta la reforma laboral lo hace precisamente para que pase lo que está pasando

y para que bajen los salarios devaluación interna lo llaman

la reducción de los salarios es una estrategia consciente y premeditada

frontalmente con el modelo que décimos teóricamente defender yo creo que la mayoría de los partidos políticos representados en esta cámara que es un modelo socio económico el propio el modelo de este país

y con una mano de obra cualificada y además bien pagada

política a madrid los trabajadores y trabajadoras y también nuestro modelo productivo konponbidea euskal herrian lan harremanak arautzetik

empleo decente necesitamos empleo decente empleo estable

y necesitamos recuperar una negociación colectiva que dé pie a esa realidad que a día de hoy es una realidad perdida necesitamos recuperar unas relaciones laborales basadas en derechos en una negociación colectiva justa y equilibrada en un respeto a las mayorías y en la lucha contra la precariedad nos gustaría decir que ante este deterioro progresivo de las condiciones laborales de la mayoría trabajadora de este país el gobierno ha jugado un papel de observador askotan leporatu diogu gobernu honi

borondatearen alde el gobierno vasco ha sido un agente activo en este proceso de precarización

de la negociación colectiva el gobierno se ha alineado de forma expresa a favor de las tesis de la patronal y ha respaldado permanentemente todas y cada una de sus decisiones de sus declaraciones y de sus acciones una patronal que bendice públicamente

que bendice el pacto del pnv con el pp para los presupuestos

que se niega a afrontar una subida laboral que se niega y bloquea la posibilidad de una reforma fiscal una patronal que ha paralizado la negociación colectiva una patronal a la que desde este gobierno ni del anterior jamás jamás se ha establecido

hecho ningún reproche público mientras tenemos un gobierno frontalmente enfrentado a los sindicatos mayoritarios de este país con descalificaciones muy duras

tanto en la persona de su lehendakari como de algunos de sus consejeros con algunos de los sindicatos más importantes de este país tenemos un gobierno

hacer y decir todo y que en última instancia está sometida a sus intereses eta lana harremanen munduan zoritxarrez hori horrela bada zuek ez zarete

no espero ningún cambio por parte de este gobierno no espero que cambien si el señor azpiazu no ha podido

ya de antemano le ha dicho que no hay tu tía yo creo que este gobierno si no es por una fuerte presión social política y sindical no va a cambiar de bando no va a defender
los intereses de la mayoría de este país y va a seguir supeditado a confebask eskerrik asko casanova jauna

con usted en alguna de las cuestiones que ha planteado tanto en la justificación de su interpelación como en la intervención que acabamos de escuchar

participo de la preocupación por el presente y el futuro de la negociación colectiva en euskadi pienso que la crisis económica desencadenada en dos mil ocho está teniendo repercusiones en el ámbito social y político que están condicionando el sistema de bienestar social y que se había desarrollado en europa en las últimas décadas del siglo veinte soy de la opinión que

estas consecuencias tienen su origen en determinadas decisiones de índole política adoptadas por las instituciones europeas con las repercusiones sociales conocidas

la crisis ha traído consigo una destrucción de empleo que en nuestro entorno no conocíamos desde hace décadas que ha derivado en un incremento de las desigualdades poniendo en peligro

en el ámbito estatal y europeo han provocado que los trabajadores y trabajadoras hayan perdido parte de sus condiciones laborales con el ánimo de escapar de la pérdida de empleo se ha optado por la austeridad y el recorte de derechos que entre otras cosas

a los salarios y al núcleo de la negociación colectiva tengo que decirle señor casanova que la negociación colectiva es un asunto que implica a los agentes sociales

son ellos los responsables de que aquella se lleve a cabo y tenga sus frutos dicho de otra manera la negociación colectiva se sustenta en la autonomía de las partes

es en este punto donde podemos y vamos a comprometernos como más adelante explicaré

en su interpelación me insta a que realice un análisis de la negociación colectiva en euskadi

a continuación como le he reconocido anteriormente la crisis y las decisiones adoptadas para afrontarla han provocado un cambio sustancial en el modelo de relaciones laborales que teníamos en el estado y en euskadi la más importante es que esta se ha bloqueado y que ha cambiado radicalmente su sentido

de negociación sectorial territorial a favorecer el entorno de la empresa como lugar de negociación esto tiene una consecuencia irremediable

de nuestro entramado empresarial la paralización de la negociación colectiva

que hayan decaído muchos convenios que afectaban a miles de trabajadoras y trabajadores y otros miles se encuentran con convenios pendientes de negociar por diversos motivos

desde mi punto de vista sin desmerecer a los convenios que se firman en la empresa

universalidad en las mejoras se consiguen en los marcos de negociación más amplios

o de un peligro de estatalización de los convenios sino que también tienen que ver y mucho la actitud de algunos agentes sociales que operan en el espacio vasco

implicación para impulsar procesos de negociación en los ámbitos que más pueden beneficiar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras voy a coincidir nuevamente con usted en la importancia que en su explicación a la interpelación hacía en el acuerdo firmado el diecisiete de enero

más representativos de euskadi para hacer prevalecer los acuerdos que se firmen a nivel autonómico frente a los convenios estatales aunque como le he dicho anteriormente

colectiva saludamos con esperanza ese acuerdo

estamos avanzando en la línea de que cada vez sean más los trabajadores y trabajadoras que tengan la cobertura de un convenio para mejorar y asegurar sus condiciones laborales

con convenios de vigencia ordinaria en el año casi treinta mil más que a finales del año dos mil dieciséis

se nota una actividad de acuerdo en convenios que no habían manifestado en los anteriores

decaídos o pendientes de negociar el número de personas acogidas a convenio apenas se ha modificado pero lo que resalta es que hay convenios recuperados y renovados que denotan una reactivación de la capacidad negociadora por parte de los agentes sociales motivos para el optimismo pues yo creo que sí siempre y cuando avancemos

por las medidas e iniciativas que desde el gobierno vasco y concretamente desde el departamento de trabajo y justicia vamos a articular para impulsar la negociación colectiva como le he dicho

una estableciendo canales de diálogo entre los agentes sociales en este sentido creemos de suma importancia potenciar el papel del consejo de relaciones laborales de euskadi

idóneo para favorecer la negociación colectiva por nuestra parte seguimos empeñados en que el diálogo social se institucionalice en nuestra comunidad autónoma como ya comuniqué en esta misma cámara

desde mi toma de posesión me reunido con las direcciones de los cuatro sindicatos más representativos de euskadi y con confebask

entre otras cosas la importancia de que la mesa de diálogo social sea ese ámbito y que prepare el camino para lograr efectos positivos en la negociación colectiva que tengan que llevar a cabo los agentes sociales por supuesto queremos convocar esa mesa y que en ella participen todas las personas implicadas

para buscar esa salida es mediante las medidas que podemos promover como gobierno para luchar contra la precariedad laboral en un sentido amplio la lucha contra la precariedad es una herramienta para intensificar la negociación entre los agentes sociales

ya hemos puesto en marcha una campaña para revisar los contratos temporales y los de a tiempo parcial y además de manera inminente vamos a poner

para facilitar a todos los trabajadores y trabajadoras las denuncias de las irregularidades que en materia laboral pudieran cometerse al departamento de

de calidad como ha podido escuchar al inicio de la sesión plenaria para nosotros el trabajo de calidad es sinónimo de trabajo seguro pedimos a la patronal

que a la negociación colectiva incorpore elementos de mejora de las condiciones de trabajo como factor ligado a una mejor protección de la salud

y que los acuerdos alcanzados sin ella tengan aplicación también en las pequeñas

de nuestro tejido empresarial que como usted conoce dan empleo al mayor número de personas en este sentido el organismo autónomo con participación tripartita osalan está implicado en mejorar la información la formación y la inspección en materia de seguridad y salud laboral estamos convencidos de que osalan representa una herramienta importante

favorecer la participación de los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo a través de su formación en prevención de riesgos laborales vamos a potenciar que este tipo de acciones de formación

de trabajo y justicia que considero imprescindible para favorecer la negociación colectiva es la lucha contra la discriminación y las malas prácticas en el entorno laboral de cualquier tipo en resumen señor casanova mi análisis de la situación de la negociación colectiva en euskadi es que se debe mejorar

para poder hacerlo la intención del departamento de trabajo y justicia es favorecer con todos esos instrumentos a nuestro alcance el desarrollo de la misma y nuestra propuesta es que los agentes sociales

que mejoren las condiciones de trabajo de todas las personas trabajadoras eskerrik asko san josé andrea

efectivamente la existencia de empresas y empresarios como no puede ser de otra manera y está de acuerdo no solo en su existencia sino en aportar los instrumentos que

en determinados aspectos para mejorar el funcionamiento de las empresas para mejorar su competitividad y eficiencia efectivamente nosotros contra la empresa y el empresario no tenemos nada la media

vasca en este país es de cuatro coma ocho trabajadores por empresa estamos hablando de un tejido productivo fundamentalmente vasado en las pymes incluso en las empresas pequeñas incluso microempresas pero es cierto que quien lleva la voz cantante y quien aparece ante la sociedad

variopinto que es el mundo de la empresa son determinadas asociaciones que a día de hoy están jugando un papel muy determinado si las empresas crean trabajo digno

adelante lo que no puede ser es que los representantes del mundo empresarial a día de hoy a través de sus asociaciones

asociación que es confebask esté jugando un papel de lobby al servicio de los intereses no de las empresas

es donde parecen contar con el pleno respaldo del gobierno que tenemos

pero es que hay algunos agentes sociales a los que por parte de este gobierno se critica sin piedad de forma frontal y esos agentes sociales son casualmente algunos sindicatos y sin embargo a la patronal

absolutamente nunca haga lo que haga y eso puede ser por dos razones o bien porque se está de acuerdo o bien porque se tiene miedo o se está supeditado a esa patronal y yo quisiera que el gobierno que con la misma contundencia que alza la voz porque al fin y al cabo yo no puedo decir lo que el gobierno tiene que pensar o quiere pensar bueno son libres para ello pero si tiene legitimidad y se cree

cuando la patronal les dice por ejemplo no somos partidarios de subir los salarios de forma generalizada no vamos aceptar el planteamiento de quítame la reforma laboral o les metan una reforma fiscal

me he quedado con la duda porque cuando usted decía que hay algunos agentes sociales que son responsables de la negociación colectiva y no están cumpliendo su papel me hubiera gustado que terminara la frase

la lectura del gobierno vasco cuáles son ese o esos agentes

y en tal caso que dijera qué es lo que el gobierno quiere hacer baina gainera ez da nahikoa esatea lan harremanak sindikatuek eta

adibide berbera eduki genuen zure predezesorea no sé cómo definir después de lo que habéis hecho con la división

que luego no se llevaban a la práctica entonces lo que yo quisiera es en primer lugar

en defensa de los intereses de la mayoría de esta país y segundo lugar que ese discurso se llevara a la práctica pero claro igual me tenía que dirigir a esta parte de la bancada que precisamente ahora tenía cosas más importantes

señor casanova yo no he venido aquí a hablarle de lo que dicen y hacen los demás yo he venido aquí a decirle lo que mi departamento de trabajo y justicia

está haciendo y está trabajando y con la pista puesta en la calidad en el trabajo entonces

de todo tipo de nuestros trabajadores y trabajadoras es una apuesta de mi departamento y queremos paliar actuando con las competencias que tenemos

como son las políticas de austeridad la reforma laboral o la reforma de la negociación colectiva como le he dicho en mi primera intervención

a nivel provincial o autonómico son desde mi punto de vista los que mejor aseguran que se mejoren esas condiciones pero le voy a decir algo más opino que

por tanto de negociación colectiva y de diálogo social con características específicas a nivel de nuestra comunidad autónoma se lo digo con toda sinceridad

tenemos y que hace falta que consolidemos las utilicemos y hagamos que sean eficaces una de ellas

organismo de encuentro y diálogo permanente que creado y mantenido por los poderes públicos puede y debe facilitar el diálogo bipartito entre organizaciones sindicales y empresariales además en este caso es un organismo en que participan todas las organizaciones representativas

como legítimos portavoces de los colectivos que representan incapacidad para alcanzar acuerdos al último de ellos el firmado el pasado diecisiete de enero nos hemos referido

que pueden servir perfectamente para ir tejiendo el entramado que permita concluir con logros efectivos en la negociación colectiva creo que los dos niveles que le he descrito compartidos

un marco de relaciones laborales vasco que permitiría darle un carácter cualitativo y específico tenemos pues los lugares de encuentro y un acuerdo de base para empezar a trabajar por lo que tenemos

todo trabajador y trabajadora pueda acogerse a un convenio firmado en esta comunidad soy consciente de las dificultades y las reticencias que algunos de los actores principales

no vamos a dejar de insistir y favorecer que se abran esas vías de concertación sinceramente creo que lo que necesita es reforzar la voluntad de acuerdo y ponerse a trabajar en ello

o de invasión progresiva de los convenios estatales en el ámbito vasco de las relaciones laborales la estatalización de los convenios colectivos que está teniendo lugar

diría aún más no es la causa principal de los datos del consejo de relaciones laborales de los últimos ocho o nueve años

ha sido un hecho habitual cuya consecuencia ha sido el decaimiento de muchos convenios colectivos sectoriales del ámbito vasco ya sean provinciales o autonómicos convirtiéndose en muchos casos los convenios de ámbito estatal en la única referencia y en la única cobertura de los trabajadores y trabajadoras en euskadi por lo tanto si partimos de la premisa que es importante y beneficioso

lo que hay que posibilitar es que los convenios se firmen en euskadi de otra parte conviene recordar que el acuerdo interconfederal suscrito por los agentes sociales el pasado diecisiete de enero

el acuerdo fue posible en el año dos mil doce primero y en el año dos mil catorce después pero como usted bien sabe la negativa de alguno de los agentes sociales a suscribirlo en aquellos momentos imposibilitó que se pudiese blindar la negociación colectiva sectorial de ámbito vasco